ikusi behar dugu zein izan den espainiar estatuaren erreakzioa su reacción ha sido llevar al representante legítimo elegido por los catalanes y por las catalanas a los tribunales por intentar consultar a su ciudadanía

porque el estado español no reconoce ni reconocerá la identidad nacional de cataluña ni su derecho a decidir ni tampoco reconocerá el derecho a consultar que le compete al presidente mas a su propia ciudadanía a su propia sociedad eta

halako galderari eta gure erantzuna argia eta garbia da no queremos no queremos negociar las condiciones de nuestra dependencia

dignificar nuestras condiciones de subordinación y sumisión porque no queremos ser subordinados a nadie queremos decidir como nación

que aspiramos a ser y en este momento histórico en el que vivimos donde cataluña toma su camino definitivo a la libertad le pedimos a la sociedad vasca al pueblo vasco

y le pedimos también cómo no a sus representantes políticos institucionales que estén que estemos a la altura del momento histórico que vivimos eskerrik asko

euskadin ere reitero somos contrarios a la judicialización de la política

evidenciar la falta de capacidad y respuesta política del gobierno español y volvemos a insistir en que las soluciones políticas

insisto no desde la cerrazón y la imposición del gobierno español pero tampoco desde aseveraciones tan taxativas

señor lehendakari señores consejeros señorías señora consejera hace poco más de un año le preguntábamos por las consecuencias

de la empresa aldanondo tenía en esta comunidad autónoma

usted señora consejera nos decía hace aproximadamente un año que estaban abordando distintas actuaciones para conseguir que esta empresa pueda ser reflotada funcione y pague lo que debe cuál es la situación en este momento señora

jaso beharrekoak hemos seguido de cerca la evolución de la empresa como no podía ser de otra manera y hemos tratado de buscar diferentes soluciones pero sobre todo tratando de buscar solución a esas deudas que se mantenían con los pastores porque entendemos que eran la parte más débil de la cadena

son parte importante de esa producción lechera que se estaba utilizando y además es una forma de dar salida a algo que no pueden utilizar en sus propias explotaciones por tanto dentro de las conversaciones de todas las actuaciones que se han ido realizando esta ha sido la prioridad respetando la confidencialidad de la situación de las diferentes negociaciones y de cómo se está trabajando podemos decir que aldanondo se está reestructurando aldanondo está renegociando su deuda está buscando un nuevo socio ha habido algunos

pero en lo que se refiere a la deuda contraída con los pastores le tengo que decir que

de la deuda de dos mil trece ha sido abonado ya y el diez por ciento de la deuda contraída en dos mil catorce también ha sido abonada por tanto a treinta y uno de agosto de este mismo año

y además hemos conseguido que en la campaña de dos mil quince la recogida de la leche se haya

los pastores están cobrando puntualmente por el importe económico correspondiente a la entrega de la leche que están realizando eskerrik asko

efectivamente señora consejera aldanando fue una empresa impulsada desde el gobierno vasco como empresa tractora del sector primario concretamente del sector ovino

que recogía la leche de aquellos pastores adscritos a la denominación de origen idiazabal

construir una nueva quesería quesería de volumen desproporcionado inversión impresionante entorno a dieciocho millónes de euros por lo que recibió ayudas muy importantes del gobierno vasco creemos que sin estudio de viabilidad porque sino no se hubiese dado la situación que se ha dado y si había estudio de viabilidad no se entiende la situación

más de cuatro millónes de euros de ayudas directas tres millónes en créditos reintegrables que no devuelven en plazo no sé cómo está la situación d estos créditos eso lo que sabemos oficialmente no voy a comentar lo que se habla extraoficialmente verdad desde hace un tiempo entra en crisis su viabilidad es dudosa y hoy todo el entorno

entienden que la situación ya no es dudosa es caótica por lo tanto no sé cuál es ese tipo de reestructuración que la señora consejera nos dice que se está produciendo nosotros entendemos que es muy importante la situación solucionar o dar una solución a la situación que están atravesando los ganaderos que llevan muchísimo tiempo sin cobrar esperemos que esta

nosotros meteremos una enmienda en los presupuestos que recoja esta cantidad y se haga ya creemos

fiar la solución de este tema a la situación o como se solucione la situación de la empresa aldanondo

que además no tienen herramientas para recurrir sí tiene la administración en caso de que no se devuelvan

recursos tienen por lo tanto señora consejera nos gustaría

esta reestructuración que usted dice que se está dando nos la concrete y nos dé certezas de que esto tiene viabilidad porque hoy

no hay viabilidad de esta empresa nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

entiendo que quiera usted hacer una crítica política de la empresa de cómo se constituyó lo entiendo perfectamente está usted en su derecho pero estamos hablando de la deuda de los pastores de la deuda que acarreamos y le he dicho

se ha abonado toda la parte de dos mil trece y se ha abonado el diez por ciento de bi mila hamalau dos mil quince no existe duda porque hemos encontrado otro camino se está reestructurando

buscando otra entidad financiera por tanto señora lópez de ocariz estamos haciendo lo que hay que hacer y la empresa lo está haciendo lo que se habla en distintos lugares creo que no nos toca a nosotros hablarlo tenemos que tener un poquito más de rigor en el hablar y en el actuar

a poner una enmienda al gobierno para que el gobierno sea quien abone las deudas lo va a hacer solo con los ganaderos o con todas las deudas de todas las empresas que hay en el país porque claro

de este país me temo que tenemos que hacer las cosas con un poquito más de seriedad y buscando unas soluciones a largo plazo y no poniendo parches y tratando de hacer enmiendas que de verdad

es cierto que el grupo aernnova anunció a finales de julio que iba a presentar un ere para ciento treinta trabajadores de la empresa de

se trata de una de las nueve empresas del grupo como bien decía y es una decisión empresarial que hemos mantenido relaciones con la empresa nos lo ha explicado pero también con el comité de empresa y hemos escuchado

ambas partes hemos mantenido múltiples reuniones tanto con el comité de empresa como con la dirección de la misma hemos evaluado la situación y hemos pedido a la empresa como siempre en estos casos que explore cualquier vía alternativa

o que en su caso en el caso de presentarlo se minimicen los efectos y

vías no traumáticas como siempre se hace en cualquier otro caso en este caso estamos a disposición tanto de la empresa y así lo hemos hecho saber como del comité de empresa para analizar estas vías
que puede poner la empresa dado que se trata de un grupo empresarial donde esta es una de las nueve empresas eskerrik asko tapia andrea arrondo andrea

ha ido reduciendo el número de trabajadores y trabajadoras en araba

en una operación perfectamente planificada y que ha contado con el beneplácito y la alabanza del gobierno vasco

ha aplaudido esa internacionalización de la empresa a pesar de que ello supone la pérdida de puestos de trabajo en araba

apoyaba incondicionalmente a aernnova la empresa presentaba un ere en gasteiz

se anuncia la intención de salir a bolsa en el primer semestre de dos mil dieciséis y en el presente ejercicio ha tenido

damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor consejero

esta mañana hemos oído hablar mucho del cupo del concierto económico y hay otra ley

que es la ley de aportaciones que es el reparto de los ingresos que se derivan de ese concierto económico y que se reparten entre el gobierno vasco las diputaciones forales y los ayuntamientos hoy está vigente la ley dos barra dos mil siete

de metodología y distribución de recursos lo que se llama la ley de aportaciones para el periodo aplicable dos mil siete dos mil once y si bien esta ley por una disposición

que se introdujo como novedad decía que excepcionalmente

no se aprobara una nueva pues esta ley seguiría vigente para el ejercicio dos mil doce y siguientes que es en la que estamos

ley de aportaciones hoy nueva para este periodo no le podemos echar la culpa a nadie de madrid ni de ningún otro sitio ni a ningún extraterrestre esto es una cosa interna de esta comunidad autónoma esto es una cosa que en fin está previsto que en el consejo vasco de finanzas

y traigan a esta cámara un proyecto de ley y evidentemente dentro de los planes de este gobierno estaba el plantear y el traer

queda un año en el mejor de los casos en el mes de junio julio perdón algún diputado general ya dijo que no hacía falta bueno el otro día han tenido ustedes consejo vasco de finanzas con lo cual pues bueno la interpelación queda muy de actualidad porque algún otro diputado general ha dicho que ya

que perjudica unas diputaciones o a otras pero bueno

que por lo visto a pesar de todos ser en este caso del mismo partido político que el señor consejero uno esperaría que se pusieran de acuerdo cuanto antes en traer la ley de aportaciones que corresponde a este periodo

esta interpelación usted sabe que a nosotros no nos gustaba la que vino y no la apoyamos por ese mismo motivo entre otras cosas porque hay que recordar que la discusión no era si una diputación

pero que salían perjudicadas porque técnicamente estaba mal pero es que se mantuvo todas las ineficiencias técnicas

en las leyes anteriores y los problemas territoriales surgían

y se mantuvieron hasta el punto

para la que las descompensaciones que provocaba la propia metodología de la ley no perjudicara demasiado a algunos de los territorios y se hizo la engañifa

que digamos es el que fija para que todos nos entendamos qué porcentaje de recursos se lleva el gobierno vasco se bajó

que se iba a destinar más dinero a ayuntamientos y diputaciones cuando en realidad se destinaba el mismo porque era el dinero que se quitaba de las recaudaciones del iae y era esa simple compensación

nosotros en este caso no dependemos de nadie dependemos de nosotros mismos de nuestras instituciones todas gobernadas por el mismo partido político

si es intención de este gobierno traer la ley de aportaciones que corresponde o vamos a seguir

en prórroga con una ley que parece que ya nadie está de acuerdo con ella ni si quiera los dirigentes de su propio partido eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko

muchas gracias señora presidenta yo pensaba que había hecho una interpelación muy simple era si el gobierno vasco iba a traer
la nueva ley aportaciones y yo ya sé que

hace no tanto tiempo las cuatro instituciones que se tienen que poner de acuerdo en cada uno gobernaba un partido político

por el gobierno de turno llegar a ese acuerdo ahora resulta que todas están en manos del mismo partido y por lo que le escucho al señor consejero ahora es más complicado porque claro a ver si luego aquí en el parlamento no se va a aprobar

no dejo de salir de mi asombro yo no le estoy discutiendo los pilares de que hay que aportarse una renta ni el esfuerzo fiscal

de reparto de los ingresos fiscales después de pagar el cupo después de pagar el cupo

muy importantes y además cada vez más porque cada vez son con los que más se recauda y se recauda bastante menos

que teníamos que tener ya la nueva ley de aportaciones hace cuatro años no está ahí nosotros le hemos interpelado para ver si este gobierno va

haciendo algo o está intentando o están negociando o están haciendo algo para que haya una

diciendo unos que sí y otros que no unos que hay que

pero eso nos consta por declaraciones en la prensa no nos consta absolutamente nada más y yo lo de vamos a ver y la ley del cupo es muy importante pero al final la ley del cupo es decir bueno mientras no haya ley del cupo no vamos a tener ley de aportaciones pues

pero tampoco puede ser eso así es decir la ley del cupo lo que regula es el cupo que hay que pagar y aquí estamos hablando de la distribución del resto de los recursos

entre las demás instituciones que no es solo la del gobierno vasco porque estamos hablando también de los recursos

de los impuestos de los ciudadanos que pagamos sale lo mismo el cupo para el estado la aportación para el gobierno vasco y el dinero restante que queda para diputaciones y ayuntamientos

muy importante también nos hubiera gustado que no se hubiera planteado lo que se planteó en la última que se aprobó y a lo mejor todo hubiera sido más simple y más sencillo

de aquella ultima ley del cupo que se aprobó y lo sabe usted y lo sé yo y por eso yo le tengo que reiterar mi interpelación es decir este gobierno va a traer un proyecto de ley de aportaciones no ya para los periodos pasados que se nos han pasado en fin

porque como gobierna él en las cuatro instituciones que se tienen que poner de acuerdo es incapaz de hacerlo eskerrik asko damborenea jauna

decíamos ayer que el gobierno estaba enterrando las políticas activas de empleo

y del gobierno vasco y que si no hubiera sido por nuestro paso por el gobierno con toda seguridad hoy no habría políticas activas

cuando el señor lehendakari hablaba de las políticas activas pasivas y que por tanto explicación por la cual las políticas activas

claro esto puede parecer propagandístico electoral pero a la vista de los antecedentes señor consejero creo que es rigurosamente objetivo a la vista de los antecedentes y a la vista del momento presente porque

el registro de los centros especiales de empleo cuestión que ya se planteó en el año dos mil trece se trató en un pleno de dos mil catorce

a crear el registro de los centros especiales de empleo han pasado dos años ya dos años en este tiempo el gobierno nos ha dicho infinidad de cosas que por cierto

unas y otras en primer lugar el real decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno barra dos mil diez sobre traspaso de

ejecutivas en materia de integración de las personas con discapacidad

es decir funciones ejecutivas de la legislación y de desarrollo de la legislación laboral

respuestas que nos ha venido dando el gobierno a través del tiempo es que había que crear un marco propio que estaban pensando pues en fin en un ámbito pues no sé de qué naturaleza pero que esto estaba impidiendo llevar adelante lo que en otras comunidades autónomas se ha hecho

el decreto correspondiente para crear el registro de centros especiales de empleo pero aquí no aquí llevamos ya como digo dos años pero claro

en el cargo en junio del dos mil catorce decía

nos encontramos con que ese borrador que al final mandaron por cierto borrador que ya lleva un año elaborado

el grupo parlamentario euskal herria bildu entonces mandan en un borrador de decreto hace ya un año

citan el marco normativo claro la ley general de derechos de las personas con discapacidad real decreto legislativo uno barra dos mil trece luego

y anteriores a esta ley de dos mil trece estaba la ley de inserción de mil novecientos ochenta y dos es decir marco normativo había y lo que el gobierno vasco tenía que hacer era

como el que hacen otras comunidades autónomas para crear ese registro el señor aburto también

en el momento en el que le preguntábamos en junio del año pasado por qué se daba este retraso y

no confesables eso parece que le molestó pero es que realmente no puedo pensar señor consejero que el gobierno

alguna razón que se me escapa que bien me gustaría saber porque claro

que cuando cojo ese borrador y lo comparo con otros decretos de otras autonomías

vienen a hablar de lo mismo vienen a hablar de lo mismo el artículo uno habla del objeto en otros casos habla de la creación

clases la forma de solicitud de inscripción en el registro cosas normales y este gobierno sigue

sin aclararnos realmente porque luego hubo como sabe hace poco una

suya y de su equipo en la comisión de empleo y a propósito de la misma hubo algunas manifestaciones que me llevaron a preguntar sobre este asunto y el director de servicios en fin me dio una respuesta que todavía me dejó más confuso porque

si es que ese registro ya se había creado y me dijo que no que bueno que no lo sabía exactamente pero que en fin que era una cuestión de orden interno que lo llamaban así en el orden interno pero que a mí me pareció realmente impropio de un gobierno serio que un asunto de este tipo se pueda mantener en estas circunstancias señor consejero porque

centros especiales de empleo tengan ánimo de lucro o no tengan ánimo de lucro

la ley general de las personas con discapacidad y de sus derechos ya dice

el señor itxaso sino que ese marco normativo ya está por lo tanto en este asunto señor consejero en fin no sé qué me va a decir al respecto porque yo la pregunta que le hago es para cuándo y la interpelación como a nadie

como misión traducirse en una moción exigiéndole una vez más que lo cree porque que pregunte y que trate de indagar

parece esto a los centros especiales de empleo ya existentes pues bien me parece bien son los que tienen experiencia y además en euskadi hay que decir que tenemos realmente

empresas modélicas y que son un ejemplo a seguir en esta materia pero son empresas que están inscritas cuando funcionaba

a no ser que se dote y se cree ese registro concreto para los centros especiales de empleo entonces claro están preguntando y están tratando de averiguar

los que ya están operando y nosotros preguntamos por qué no se crea el registro para que puedan operar otros que potencialmente pudieran hacerlo otros que hoy no son

pues no lo sé a día de hoy porque cuando esto se planteó en su momento surgía desde luego de iniciativas de base social que trataban de que en este parlamento

más iniciativas que persiguen el mismo fin pero lo cierto es que el gobierno sobre esta materia no ha hecho nada yo lamento ser severo en este juicio que hago señor consejero porque sé que usted en fin se ha incorporado al gobierno

no todo este parón o toda esta situación

pero ciertamente como miembro del gobierno le tengo que decir señor consejero nos parece que se está vacilando mucho con este asunto dando una serie de explicaciones que no tienen

mucha coherencia y por lo tanto

cuándo van a crear el registro para centros especiales de empleo eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko

legebiltzarkideok egun on señor itxaso voy a empezar

no le va a satisfacer mi intervención casi nunca satisfacen las intervenciones

pero bueno vamos a tratar de responder con lo que sabemos los centros especiales son fórmulas

con familiares que tienen como objetivo principal la integración laboral y por lo tanto social de personas con discapacidad

este gobierno este parlamento este país ha dado muestras suficientes repetidas veces de tener una especial dedicación a estos centros especiales de empleo

ante ayer abrir o estar en la inauguración de un supermercado con discapacitados hecho a través de un centro especial de empleo entre gureak y eroski por lo tanto

en el gobierno en el parlamento en el país creo que este es un asunto que

con cariño con dedicación especial porque sabemos que estamos hablando de personas discapacitadas que necesitan una integración especial y un esfuerzo especial para su integración en el empleo

con un mínimo del setenta por ciento de trabajadores con discapacidad y solicitar la calificación a la administración competente estos centros vienen trabajando con estas personas con discapacidad desde hace muchos años y ya se recogía en la lismi del año ochenta y dos y luego el artículo ciento cuarenta y nueve de la constitución

a través de un registro y también se preveía la creación de registros autonómicos por parte de las comunidades autónomas en el artículo siete decía

su calificación e inscripción en el registro de centros que la administración central o en su caso

de competencias a falta de normativa autonómica se está aplicando

este gobierno tiene previsto elaborar una normativa propia a través de un decreto donde se regule la creación y el funcionamiento del registro de centros especiales de empleo a día de hoy

es gestionado por lanbide la función relativa a la calificación de centros especiales de empleo y su registro fue traspasada a la comunidad autónoma vasca mediante

a la comunidad en materia de ejecución de legislación laboral del ámbito del trabajo el empleo la formación profesional que realiza el servicio público de empleo y usted ha citado el apartado b artículo dosc del citado acuerdo y no lo voy a repetir aquí porque me parece que es

asumió el ejercicio de esta función desde el inicio de su actividad y aun no mencionándose expresamente se entiende incluida en la función de lanbide gestionar los programas de empleo

en este organismo autónomo se recoge que y dice textualmente gestionar programas de empleo de formación para el empleo

creación de empresas y dentro de su estructura es la dirección de activación laboral la que

este registro pero le avanzo los pasos que se han ido dando en la elaboración de este decreto de registros de centros especiales de empleo

especiales de empleo y la regulación del procedimiento de calificación e inscripción se aprobó por acuerdo del consejo de administración de lanbide en la sesión de veintidós de julio de dos mil quince hace dos meses se está ultimando la documentación inicial del expediente para su tramitación

la semana del diecinueve de octubre se prevé que el consejero de empleo este consejero de empleo dicte la orden de inicio de procedimiento

la orden de aprobación previa del mismo y una vez se complete con el informe jurídico de la dirección de servicios generales de lanbide

última semana de octubre comenzará el trámite de audiencia a aquellos cuyos intereses se puedan ver afectados así como a las organizaciones sindicales y empresariales y se solicitarán los correspondientes informes que en la orden de inicio se dispongan

bueno señor consejero le voy a decir con franqueza que a mí lo que más satisfacción me va a causar es ver

lo que me va a causar verdadera satisfacción pero no porque sea algo que hayamos impulsado hayamos estado detrás de ello y lo vayan a sacar a rebufo de la

y lo que le he dicho en la primera intervención señor consejero cuando yo interpelé por primera vez a su predecesor

él afirmaba entonces que para dos mil catorce estaría pero cuando responde el gobierno a preguntas del grupo euskal herria bildu para cuándo prevé el gobierno la creación del registro y en consecuencia el cumplimiento del mandato parlamentario responden diciendo como decíamos es muy complejo elaborar un registro sin la referencia normativa de la ley pues sabe lo que ha hecho usted ahora

es decir que es que el gobierno se contradice cuando dice que estamos buscando un marco propio pero si ha citado usted el marco sobre el cual el decreto de transferencia la ley general de derechos

lo que no puede ser es que hace un año hace un año enviaron

acompañando a esta respuesta el borrador del decreto es decir no llegó a los grupos

la propuesta que tiene el gobierno en esta materia no había que encontrarla y localizarla en respuestas a otros grupos en mi caso y tratar

pero ciertamente contradicción por una parte en el dos mil catorce

señor consejero es que realmente no creo que sea una exageración ni que sea

afirmar que este gobierno en políticas activas de empleo va muy mal

de todo jaez explicando dentro de lo que es la administración

sí pero esas cosas ocurren señor consejero incluso cuando los gobiernos están en funciones es decir cuando los gobiernos no tienen casi actividad ejecutiva

nosotros preguntamos por cuál es la acción de gobierno cuál es el nervio político que emplean en las cosas y aquí venimos a hablar de centros especiales de empleo y su registro para que puedan operar

es sintomático no es necesario hablar de otros asuntos que no estarían en el objeto de este punto pero es que esto representa como poco como nada cuál es la actitud que el gobierno tiene en materia de políticas activas de empleo esto es un ejemplo que se reproduce en otras políticas

pero es que esta refleja como nada lo que es la inacción pero claro no la inacción como he dicho anteriormente de la parálisis por el análisis yo creo que alguna intención tiene que haber para que hombre un borrador que llegó en octubre del año pasado es decir un año que se iba a consultar con los agentes pero bueno tanto tiempo puede

ya están inscritas y no depende de este nuevo borrador su inscripción puede que en orden a modificar algunas cuestiones pues sí que les afectaría el decreto una vez que se alumbre pero ya pueden operar plenamente pueden acogerse a las ayudas porque además el acuerdo

a ejecutar hablaba de hacerlo con un efecto retroactivo para que las órdenes subvencionales pudieran también acogerse a ellas aquellos que se inscribieran una vez que el registro se habilitara ha habido órdenes subvenciónales no hay

en la pomada y por lo tanto como le digo señor consejero la satisfacción vendrá cuando eso se cree aunque es verdad que

más vale tarde que nunca pero creo que un gobierno tendría que mostrar un mayor ejemplo de diligencia y obrar con mayor prontitud porque

de políticas activas de empleo estamos hablando de discapacitados y estamos hablando de inserción laboral temas importantes eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

que el gobierno tiene alguna intención escondida de no hacer el registro para favorecer a los que ya están y no dejar que trabajen los que pudieran estar

pues no yo ya le he mencionado anteriormente que es nuestra obligación atender las peticiones de este parlamento

lo sabe y desarrollar una normativa propia que regule la creación y el funcionamiento de este registro oficial de centros especiales de empleo a mí también me resultará satisfactorio el día que podamos decir que se ha creado

y se lo volveré a repetir que se creará le he dado fechas y que se creará pronto quiero insistirle que la realidad es que de hecho hoy a través de la dirección de activación laboral ya se viene gestionando dicho registro

a la creación del registro vasco de centros especiales de empleo y la regulación de su calificación y que una vez esté

estamos contando con la continua colaboración del tercer sector para este proceso

a favor del empleo con las personas con discapacidad también consideramos que el desarrollo de este decreto del registro de centros especiales de empleo debe ser

de un marco mucho más general donde se analicen las necesidades las oportunidades y los retos del empleo la intención de este gobierno es trabajar junto con las entidades que trabajan en torno al empleo de las personas con discapacidad en la reflexión en el análisis y en profundidad sobre el empleo de estas personas

un marco normativo que les ofrezca respuestas desde una perspectiva global a las conclusiones que se derivaran de este análisis y el hecho de tener que preparar de tener que preparar y centrarnos en la elaboración de este decreto ciertamente está posponiendo esta labor más genérica pero seguimos trabajando en esta línea yo

pero le he dado una respuesta unas fechas muy concretas y muy próximas

y usted es consciente y este parlamento es consciente que lo importante no son los registros sino los centros especiales de empleo

lo importante es el objetivo no la técnica el instrumento y ciertamente estamos atrasados

le tengo que decir también que la preocupación por los centros especiales de empleo por su promoción la preocupación por las personas con discapacidad los instrumentos que desde los presupuestos el gobierno vasco y de lanbide se

sin tratar de excluir a nadie son ejes fundamentales de nuestras políticas activas de empleo y esto no se puede poner en cuestión el registro va a ser

un instrumento que es necesario y que lo pondremos rápidamente en marcha pero es un instrumento

porque los centros especiales de empleo ciertamente están siendo atención prioritaria de este gobierno eskerrik asko

que dedicamos en este parlamento al reto inmediato que nos demandaban los ciudadanos combatir el paro y la pobreza en esta sesión aprobamos

no ha hecho sus deberes una de esas medidas era la de hacer el plan especifico de refuerzo de recursos humanos y materiales orientados a la lucha contra el fraude en la contratación

se han cubierto las plazas vacantes pendientes de transferencia a la inspección de trabajo pero no se ha aumentado la plantilla como también pidió expresamente este parlamento el diecinueve de febrero de este año y prometió el consejero de empleo y política social don juan mari aburto en el pleno del veintiocho de noviembre

abuso en la contratación temporal de una forma fraudulenta falsos autónomos o contratos a tiempo parcial abusivos consejero los datos los sabe usted mejor que yo

de la voluminosa temporalidad del empleo en euskadi se firman

y una cuarta parte de ellos se extienden a menos de siete jornadas los indefinidos apenas superan

es la realidad durante estos últimos cuatro años los ajustes se ha hecho sobre el empleo a diferencia de lo que se ha producido en otros países de la unión europea no se entiende que hablemos de recuperación económica que se debe traducir en recuperación en el empleo y que en la práctica esos puestos de trabajo recuperados se parcelen de la forma que permite

ya sabemos que su gobierno no comparte este modelo pero su gobierno tiene competencias para limitar esos efectos entre ellos crear campañas de inspección de trabajo

lacerante realidad diferentes a las que realiza la inspección estatal y que no van por ahí por ello le pregunto cuándo van a remitir un plan específico de inspección de trabajo que impida a las distintas formas fraudulentas de contratación

egia da las medidas referentes al aumento de plantilla del cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social en el país vasco ha recibido la aprobación por parte de este gobierno y se encuentra en fase de creación de la relación de puestos de trabajo

de administración pública y justicia que permitirá la dotación de seis nuevas plazas en el colectivo de inspectores de trabajo de los cuales cuatro son jefaturas de unidad del sistema de inspección

a las campañas de inspección específicas en la materia tengo que señalar que dentro de la programación anual que lleva a cabo la inspección de trabajo del país vasco que usted bien conoce para el ejercicio dos mil dieciséis de manera particular en el ámbito de la lucha contra el fraude y la precariedad laboral

tres campañas sin perjuicio de que la lucha contra el fraude realizada por la inspección de trabajo también se desarrolla de forma importante a través del control del empleo irregular que lleva a cabo la inspección de trabajo dependiente de la administración general del estado en el marco de sus competencias

después de un año no se han creado todavía esas seis plazas que se prometieron entonces eso es una realidad y me alegro que para el año dos mil dieciséis se vayan a hacer campañas específicas en esta materia soy inspectora de trabajo y conozco bien esa tarea y a mis compañeros le aseguro que mi interés es combatir esas formas fraudulentas de contratación pero para eso

y materiales suficientes y dirigir su acción ante un lugar concreto se pueden realizar campañas específicas para ello sobre el fraude en la temporalidad los planes están para establecer prioridades fijar objetivos y evaluar su funcionamiento

es sancionar a quienes se valen de esa legislación laboral para tentar directamente contra los derechos de los trabajadores las empresas deben ganar competitividad por otras vías

derechos laborales y la reducción de los salarios necesitamos un gobierno menos quejoso y más activo más decidido hay que usar todas las competencias también las que tenemos en materia de inspección para atajar esta situación que no solo empobrece a los trabajadores

por el que las cotizaciones son más bajas y condena a los trabajadores a depender ahora y en un futuro de la protección social debemos poner medidas ya

la precariedad una de ellas ciertamente son las campañas de la inspección de trabajo y le voy a detallar

primero la campaña de revisión de la contratación a tiempo parcial

será desarrollada tanto por inspectores de trabajo como por subinspectores laborales y será su objetivo el control de la contratación a tiempo parcial verificar

o si por el contrario se ha vulnerado la normativa sobre contratación y utilizar

a las indicadas en los contratos de tiempo parcial segunda campaña de control del fraude en la contratación y la finalidad de esta campaña

es determinar si las modalidades de contratación temporal que se están utilizando por las empresas se ajustan a las causas establecidas por el ordenamiento para poder realizar los mismos o si bien son abusos del ley

y el objetivo de la misma es la determinación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación temporal de los trabajadores especialmente en empresas que por el número de trabajadores contratados bajo estas modalidades o por el número de contratos celebrados se considere oportuno verificar la adecuación

y tercera y última campaña campaña de control de la discriminación en la relación laboral la campaña se iniciará por denuncia de los trabajadores o representantes legales de los mismos y la finalidad de la misma es la determinación de las condiciones laborales de los trabajadores garantizando que el salario

de acuerdo a la normativa vigente y a los convenios colectivos de aplicación

que este gobierno confía en la profesionalidad de su inspección de trabajo y que su inspección de trabajo defiende suficientemente de manera eficaz

da titulares y frases contundentes por decirlo de alguna forma con muchas puedo estar de acuerdo con alguna no

antes se ha citado lo de que las empresas pasaban de lanbide es evidente que estoy de acuerdo con usted

habrá que ponerle remedio para que eso no ocurra hay otras en las que no estoy de acuerdo

y hay otra que sin embargo sí estoy de acuerdo y es el motivo de la interpelación que fueron unas declaraciones suyas en el mes de junio

era que en el dos mil veinte podíamos estar casi sin paro

por supuesto gracias a la actividad del gobierno no podía ser de otra forma pero sobre todo gracias a algunas variables que soplaban a nuestro favor entonces esas variables positivas son los menores índices de natalidad y por lo tanto cada vez se incorporan menos vascos al mercado de trabajo y luego están las jubilaciones y las prejubilaciones de los demás

que yo estoy de acuerdo con usted con eso que está planteando pero claro la pregunta siguiente es este es el modelo que queremos

este es el modelo que queremos que cada vez haya menos gente activa y trabajando pero por eso le digo que yo no estaba de acuerdo

y aguanten porque luego tuvimos también conocimiento del informe del consejo vasco de la juventud

en el que se decían algunas cosas y yo se las voy a leer son las que son pero que dan la medida de en donde estamos y lo que está pasando

joven y los movimientos migratorios y cómo vamos perdiendo se van más jóvenes de los que vienen que sí que es un hecho que lo constatamos todos

yo creo que es más grave porque los que se van a trabajar fuera están más cualificados que los que vienen aquí y por lo tanto

ya es malo que digamos el saldo migratorio de jóvenes no sea bueno sino que además qué jóvenes que estamos exportando y qué jóvenes estamos importando o qué tipo de puestos

porque este es el tema se están creando en la comunidad autónoma o están a disposición de los jóvenes vascos

es que han venido más jóvenes provenientes de otras comunidades autónomas que los que se han ido a otras comunidades autónomas del país vasco claro es que

como todos sabemos y estos jóvenes de otras comunidades autónomas que vienen aquí vienen a puestos

o qué puestos están ocupando porque si vemos que se dice también respecto a la población activa que la evolución

y un aumento de los activos entre las personas con estudios inferiores a los universitarios

de que se está produciendo sí vienen jóvenes con menos estudios de los que se van y yo sigo diciendo que creo que es un dato malo para nosotros como comunidad autónoma y como país si luego tenemos

que es que tenemos una tasa o tienen una tasa de temporalidad superior a la media de españa según este artículo y además para poder emanciparse son los que más complicado lo tienen con mucha diferencia sobre todo

hoy hemos conocido datos de álava que no se los voy a citar porque usted también los ha visto y evidentemente

y a la vista de esto yo estoy de acuerdo con usted que podíamos terminar con el paro dentro de unos años sin hacer nada pero es evidente que ese es un sistema insostenible no ya para las pensiones y me da igual el sistema que sea nacional o el que ustedes quieran plantear pero es evidente que esa es una situación que nos lleva a ninguna parte

y por lo tanto es una posibilidad

pero lo estamos consiguiendo así entonces la pregunta la interpelación que nosotros le hacemos yo creo que es decir estoy de acuerdo

con que lleguemos al pleno empleo en el año dos mil veinte o veinticinco con estas como usted dice variables que soplan a nuestro favor que son jubilaciones prejubilaciones y los jóvenes que se van evidentemente cuando los jóvenes se van fuera y trabajan fuera nos quitamos el dato de gente apuntada en el paro

pero no creo yo que esa sea la fórmula que los vascos queremos aspirar o por lo menos nosotros en el partido popular no estamos de acuerdo

y por eso nuestra interpelación va en el sentido de si este gobierno piensa algo para que en el dos mil veinte no ya no tengamos paro sino que tengamos más vascos trabajando en el país vasco

en bastantes en algunas otras cosas yo en relación con

que no se fueran y que aguantaran creo que en este mismo parlamento he dicho que me equivoqué y creo que

es una cosa que nos dignifica porque luego he dicho también que

pueden aprender un idioma el tercero en nuestro caso después del euskera y el castellano o después del castellano y el euskera y una experiencia laboral

a trabajar aquí que vuelvan porque van a tener más facilidades de trabajar lo estoy diciendo repetidas veces

estoy animando y estamos trabajando en un borrador en una estrategia

para que nuestros jóvenes tengan los hijos que deseen no se trata tanto de una política de fomento de la natalidad sino de

y en este momento las parejas no tienen los hijos que quieren tener quieren tener dos y tienen uno porque la situación económica no se lo permite por lo tanto

podemos hacer referencia a muchas cuestiones yo me voy a fijar primero en el objeto de la pregunta

la población activa está cayendo porque cada vez hay más jubilaciones bueno le vamos a dar un poco la vuelta por lo menos a los datos fijémonos primero en la afiliación

la afiliación a la seguridad social viene creciendo en los últimos meses y la ocupación está creciendo en euskadi la ocupación está creciendo en euskadi no solo hay

la ocupación neta está creciendo en euskadi el mercado laboral mayor el número medio de afiliados en alta fue superior en septiembre incluso a agosto un dato absolutamente inhabitual crecimos en seis mil ciento dieciséis afiliados más

el mayor incremento de los últimos diez años y eso es claramente incremento de ocupación es el mejor dato seguramente según ese mismo dato nuestra comunidad autónoma tiene ochocientos noventa y uno mil quinientos veinticinco trabajadores afiliados a la seguridad social son

un dos coma quince más luego no estamos solo aumentando datos porque se jubila más gente o porque nos entra menos gente no hay más población activa

y ese paro se ha reducido en el último mes en pocos pero es muy significativo porque es el mes de septiembre en trescientos cuarenta y siete pero en total tenemos catorce mil ciento quince personas desempleadas menos que en dos mil catorce el mismo mes

a la seguridad social y esos datos no son fruto de la casualidad la situación económica en euskadi sigue siendo dura muy dura para muchas familias en especial para estos más de ciento cincuenta y cinco mil parados y para los más de ochenta mil parados

en esa situación los efectos de la crisis de la doble recesión vivida recientemente se notan y se notan mucho pero los indicadores económicos

que la economía ahora crece no sé por qué tenemos tanto interés en decir que españa va bien y que euskadi va mal este crecimiento en euskadi

según los últimos datos del eustat el instituto vasco de estadística el producto interior bruto

un crecimiento interanual del dos coma siete por ciento el crecimiento interanual de la afiliación es bastante parecido el dos coma uno por ciento todos sabemos que el empleo crece un poco por debajo o bastante por debajo últimamente que lo que es el incremento de la actividad económica y como apunte el gobierno vasco prevé un crecimiento del pib

ejercicio la economía vasca se mueve y lo reflejan los datos de crecimiento de actividad económica y del mercado laboral

la tendencia es al alza clara hay otros indicadores objetivos que también hablan de mejora económica

el consumo las ventas de viviendas a las que usted ha hecho referencia los vehículos entre otros nuestro pib ha crecido lo he dicho trimestre a trimestre y del mismo modo los saldos interanuales desde diciembre de dos mil trece refieren una reducción del desempleo

es positivo cada vez hay menos parados con una tendencia cada vez mayor a ampliar la distancia con la situación del mismo mes del año anterior

que en septiembre de dos mil catorce un descenso del ocho coma treinta y tres que es el mejor balance interanual desde diciembre de dos mil trece y mejor balance

porque creo que es importante resaltar que desde septiembre del dos mil siete es decir desde el último septiembre anterior a la crisis el paro no se había reducido en el noveno mes del año durante ese tiempo antes de la crisis lo habitual era

el mercado laboral se recuperase del bache que suponía el parón de la actividad económica propia del mes de agosto pero en los últimos años de crisis esto no había sido así y la verdad es que para nosotros ha sido una muy agradable sorpresa vamos a esperar

pero solo estoy esgrimiendo algunos datos de lo que ya ha ocurrido

no cualitativas ahora no estoy haciendo valoraciones que gustan o no gustan titulares afortunados o menos afortunados son cifras cantidades y este gobierno es consciente y termino esta primera intervención de que esta contratación a la que estoy haciendo referencia

un factor diferencial por otro lado ya me gustaría que lo fuese con el conjunto del estado solo el siete por ciento de nuestros contratos realizados en este año son indefinidos yo creo que tenemos que hacer mucho

en este campo con el consejo vasco de juventud

bueno primero habrá que decir que los datos que citaron ellos en la comparecencia que tuvieron hubo una mezcla total

del consejo de juventud español y de los datos que ofrece el consejo vasco de juventud después

jóvenes vascos eran siendo malos mejores los datos de la juventud vasca que los datos de la juventud española pero le voy a decir una cosa más también

con el consejo vasco de juventud todavía anteayer y según ellos dicen en los últimos quince años solo han tenido

dos reuniones con un consejero de empleo y las dos han sido en este gobierno eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta yo estoy de acuerdo en este caso con la rectificación de su frase de que es bueno que los jóvenes vayan fuera pero claro para luego volver aquí y poder trabajar aquí

y conozco alguna medida que ha hecho el gobierno para intentar que algunos de esos jóvenes vuelvan aquí y dentro de unos meses habrá que preguntarle al gobierno

qué efectividad ha tenido esa medida que aprobó y aportó usted me dice que está haciendo un borrador de

para que los jóvenes tengan los hijos que quieran y a mí me parece muy bien supongo que

hay un previo porque los jóvenes vascos con ese mismo informe son los que no pueden acceder a una vivienda entonces

estoy hablando de una vivienda ya sea en compra o en alquiler y eso también se refleja en ese informe entonces claro yo parto de la base está muy bien hacer un borrador para que tengan los hijos que quieran pero en algún sitio entonces supongo que habrá que adoptar medidas previas en materia de vivienda para que esos jóvenes

es que son los últimos en poder emanciparse también de toda españa con independencia de que los datos o se viva mejor aquí que en otros sitios de españa usted me ha citado los datos de septiembre y yo estoy encantado con los datos que hemos tenido en septiembre porque han sido espectaculares

en el mes de agosto se destruyó todo el empleo industrial que se había creado todo el año

y ese es un dato de agosto y ese es un mal dato muy malo porque además hablamos

que es el importante y el que supongo que todos aspiramos a que se cree porque ese induce otros empleos

en sectores como el de servicios y vamos a ver yo no he dicho que españa va bien y euskadi

vamos regular en todo evidentemente gracias a las políticas de mariano rajoy en estos cuatro años por cierto en solitario en todo

relativamente relativamente porque evidentemente nadie nos gustaría primero estar como estábamos hace tres años o cuatro años y nadie queremos estar como estamos ahora ni con el empleo como usted dice que es de baja calidad no lo siguiente

para muchos jóvenes sí y usted me podrá decir eso es culpa de la reforma laboral a lo mejor sin la reforma laboral no había ninguno no habría ninguno porque otra de sus frases

les diga a los jóvenes que tienen que rechazar determinados empleos ahora ya dice que se pueden ir que le parece bien que salgan afuera pues bien

que lo puede decir y lo puede hacer pero yo no sé si lo más conveniente es rechazar empleos como usted ha planteado

es que si el gobierno vasco tal como nos ha anunciado hoy aquí

infancia para que nuestros jóvenes puedan tener los hijos que quieran

que ahora que tenemos políticas activas de empleo que son las importantes que hemos sido la última comunidad autónoma en tenerlas ocho años después de que las tenían todas las comunidades autónomas

no las quería asumir y cuando hubo un cambio de gobierno con el partido socialista un primer acuerdo que nosotros llevamos con ellos era que había que trasferir y había que llegar al acuerdo con las políticas activas de empleo

y eso es lanbide y ese es el instrumento que tiene este gobierno y eso es lo que tendría que funcionar bien y tendríamos que intentar conseguir que como dijo el señor consejero las empresas pasan de lanbide no solo que dejen de pasar sino que estén llamando porque lanbide funciona bien

señor damborenea insisto que todavía tenemos mucho trabajo que hacer

como se conoce que he dicho muchas cosas en estos siete meses pues no me acuerdo si he dicho que

lo habré podido insinuar o se habrá podido recoger así pero lo que sí habré querido decir ciertamente

varias oportunidades de empleo para que así se puedan quedar con el mejor y rechazar con los que son malos y muy malos en cualquier caso

trasmitir imagen de autocomplacencia la situación del mercado laboral sigue siendo

que todas las personas tengan acceso a un trabajo digno sigue siendo nuestro objetivo como país que la tasa de paro sigue siendo simplemente demasiado alto es evidente

que nos dará una foto fija de la realidad de los tres meses estivales ya no hablaremos de agosto de septiembre bueno hablaremos ya de un dato más consolidado pero en cualquier caso la tasa

sobre todo los de larga duración nos tienen que preocupar nos preocupan a todos muy especialmente nos ocupan porquela responsabilidad del gobierno

siempre es complicado realizar estimaciones y más en un ámbito donde los cada vez más acelerados avances tecnológicos y los efectos de la globalización inciden de manera poco previsible y drásticamente más de una vez he oído decir que los economistas somos economistas forenses porque solo sabemos

predecir lo que va a pasar yo sí soy economista y también me considero

sin embargo y con todas las cautelas sí voy a aportar algunos datos con los que el gabinete de prospección de lanbide trabaja y que nos ayuden a planificar escenarios dentro

de actuación en políticas activas de empleo entre dos mil catorce y dos mil veinticuatro usted ha hecho mención la población de la comunidad autónoma vasca va a descender

que a veces nos equivocamos en las predicciones y disminuirá la población activa de acuerdo a las proyecciones demográficas del eustat también

y a fin de mitigar el descenso de esta población activa pues el conjunto de los países de la unión europea

medidas diferentes en distintos ámbitos además tenemos que tener en cuenta el nivel de envejecimiento de nuestra población pero este nivel

responsabilidad de nuestro gobierno evidentemente sino en todo caso de nuestras culturas el gabinete de lanbide prevé que para este periodo necesitaremos

con la consolidación de la recuperación económica la población extranjera comenzará a crecer a partir de dos mil quince la necesitaremos

pleno empleo hasta el año dos mil siete por lo menos algún año hasta dos mil veinticuatro en una estimación cauta la economía vasca creará

puestos de trabajo y si sumamos los puestos vacantes por relevo generacional que es el empleo de sustitución y los nuevos empleos empleo de expansión

y entonces la tasa de desempleo como decía efectivamente será

como resultado de la mejora de la situación económica y por lo tanto las previsiones con las que contamos nos indican al contrario creo de lo que usted afirma en su argumentación

porque siempre ha ocurrido así es que se producirá empleo de sustitución pero de manera más acusada por cuestiones puramente demográficas

el previsible descenso de la tasa de actividad también por motivos demográficos
se verá atemperada por un incremento de la población extranjera eskerrik asko eskerrik asko toña jauna amaitu zaizu denbora gai zerrendako

señora presidenta señoras y señores parlamentarios consejeros consejeras

con una cuestión que ya hemos hablado más veces en esta cámara porque es un proyecto muy importante cultural vasco español

dos mil dieciséis y alguna cuestión es necesaria aportar estamos

capital europea de la cultura dos mil dieciséis la gran duda ha sido la participación de financiación

ha habido muchas más dudas porque bildu nos tenía desde luego en la duda permanente en relación con esta cuestión pero bueno en este momento

que se anunciaba que varias empresas medianas empresas

para lo que han constituido la red innova dos mil dieciséis

del proyecto de capitalidad cultural al que pueden adherirse otras compañías previsiblemente y por eso

en ese tema de la financiación privada vale es un esfuerzo importante son una serie de empresas que se implican cuarenta y dos mil euros es una cantidad muy pequeña en relación con lo presupuestado o

económica privada en san sebastián dos mil dieciséis pero bueno ese es el esfuerzo que hay que agradecer desde aquí a esa red de empresas

pero falta mucho más por hacer por lo que le preguntamos a usted estamos en el parlamento vasco y como miembro del patronato

cómo está el tema de la financiación privada a día de hoy es decir quedan dos meses y queremos hablar de este tema con posterioridad

en comisión hablaremos de más cosas eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

ejemplo de ello es la aportación económica realizada por catorce medianas y pequeñas empresas guipuzcoanas que usted mismo ha mencionado un total de cuarenta y dos mil euros

hacerles partícipes del proyecto y trasladarles la oportunidad de unirse a él

así pues estamos comenzando a recoger los frutos del trabajo realizado señor barrio

gracias presidenta gracias consejera efectivamente por eso el evento realizado ayer todos lo hemos visto por los medios de comunicación fundamentalmente por medios guipuzcoanos

un elemento de trabajo un elemento que se tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo porque a dos meses hacer una cena para ligar a las empresas está bien

lamentable de bildu en todo este proyecto las expectativas eesde el ayuntamiento de san sebastián se han incumplido sí sí déjenme hablar ningún esfuerzo
en la búsqueda de financiación mesedez isiltasuna desidia e irresponsabilidad a seis meses

no existía ningún plan de financiación privada para san sebastián

tenían que ser cuatro millónes de euros lo que la financiación privada iba a aportar a san sebastián dos mil dieciséis ha sido una desidia completa bueno pero sí que le he preguntamos al gobierno es decir que quedan dos meses

y la cena qué conclusiones puede sacar usted de los contactos que el patronato que la dirección del proyecto está realizando en este momento

porque queremos llamar también la atención sobre esa circunstancia

vascas ayer participando de acuerdo qué contactos han tenido qué expectativas tienen qué nos puede usted decir sobre algo concreto porque es necesario

cultural del tema de programa y del tema de la participación de los eventos de las exposiciones pero sí que queremos hoy
un poco más concreta que una cena de perspectivas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

será también un importante esfuerzo de socialización se dará a conocer el programa oficial y se lanzará una campaña de comunicación muy didáctica para que todo el mundo entienda qué es la capitalidad

pero como le decía para conseguir que la capitalidad sea un verdadero éxito es

la implicación de todos es un trabajo de día a día hace una semana eran catorce empresas la semana que viene espero sinceramente sean más pero todo esto conlleva un trabajo discreto y en su momento se dará la información cuando se puede hacer es una responsabilidad compartida y aquí también debiera estar el compromiso del ministerio porque me sorprende su preocupación

es el compromiso real y financiación de las instituciones miembros del patronato nosotros estamos volcados en ello cosa que no creo sucede con el ministerio por lo que le ruego traslade

me hace una pregunta concisa me pregunta por la postura del departamento de salud sobre la elaboración de un marco legal que garantice priorizar la autonomía

una proposición en esta cámara y yo estoy seguro que usted conoce

me lo pregunta en un pleno donde tengo cuatro minutos para contestarle cuando no se ha interesado por mi posición en la comisión de derechos humanos que es donde se está tramitando el texto

efectivamente ha acudido a la comisión a solicitud del mismo ubera andrea osasun saila eusko jaurlaritzaren parte bat da eta

es reconocido por diferentes ordenamientos jurídicos internacionales siendo la declaración de derechos humanos uno de los referentes y tal y como ese derecho ha de ser salvaguardado

de la vida misma en definitiva la dignidad debe extenderse y garantizarse

en esta misma línea ha venido a reforzar la dignidad de la persona humana el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad siendo importante destacar la supeditación de la actuación sanitaria al consentimiento previo de pacientes y familias el principio de la autonomía de la persona en el ámbito de euskadi ha tenido un respaldo normativo en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos

que le presenta el responsable médico de su caso previo consentimiento escrito para la realización

y también a negarse al tratamiento lo que está materializado en diversos documentos además de los diferentes desarrollos normativos cabe mencionar por un lado

como la que es objeto de la presente proposición y por otro la estrategia en cuidados paliativos porque no hemos de olvidar que los cuidados paliativos

son uno de los pilares de la atención a los pacientes con cáncer y otros procesos crónicos en fases avanzadas y terminales este escenario

nos lleva a asumir la responsabilidad de dar nuevos pasos para avanzar y dar una mejor respuesta a las necesidades físicas emocionales y sociales

una ley que debe estar basada en el respeto de las personas sobre su propia vida su salud su enfermedad